compañeras y compañeros bueno vamos a ver cuando recibimos

esta propuesta la verdad es que la sopesamos mucho la sopesamos mucho porque lo que no hay duda es de que lo que se expresa aquí

coincide muchas veces en estos campos con ustedes por ejemplo ahora cuando usted hablaba que íbamos tarde la prisa que había estoy totalmente de acuerdo

con usted a mí hay veces que me da por llamar estos años los años perdidos porque nada cambia todo sigue igual

pues es toda su adolescencia su preadolescencia y su adolescencia los años de formación más importantes ahora bien usted cuando nos presenta esto nos lo presenta aspiraciones que la verdad me parecen encomiables pero ingenuas encomiables pero ingenuas

en el que se complete un diagnóstico compartido a ver

le voy a dar un repaso rápido y por favor como voy a hablar de los distintos grupos si alguien cree que estoy siendo injusta que me corrija luego pero vamos a ver señora ubera

una ley sobre el derecho de aprender euskera que dice cosas como

a quien no haya conseguido acreditar el be dos

cómo vamos a llegar a un diagnóstico compartido ustedes tienen una preocupación que yo comprendo es legítima por todo aquello que se relaciona con el mundo del euskera pero que les lleva a ustedes a unas posturas en las que no vamos a poder compartir diagnóstico en otras cosas sí sobre todo en la preocupación por la diversidad

el grupo de elkarrekin podemos hace una defensa legítima a ultranza

cosa que nosotros también pedimos de toda la enseñanza obligatoria pero al mismo tiempo pide sin pedir una financiación diferente

cualquier otros recursos que no sean públicos en los colegios concertados es decir pide que se cierren no pueden sobrevivir si no

una financiación distinta o no se van a poder mantener no vamos a poder llegar a un diagnóstico compartido a ver del gobierno

sí pero no no pero sí pero bueno a lo mejor pero más bien que no

no me acabo de aclarar y el grupo que apoya al gobierno

el grupo nacionalista yo creo que sencillamente tiene miedo me van a decir que no que como puedo decir que tienen ustedes miedo que más valiente que ustedes nadie

no se acaban de decantar no acaban de presentarnos algo claro algo en lo que verdaderamente ustedes creen

cuando he expuesto qué quiere nuestro grupo de la educación y les voy a hacer aquí la enumeración

a ver queremos una educación que garantice la igualdad de oportunidades para favorecer la movilidad social

que el hijo hija de personas pobres no estén condenadas a la pobreza

adineradas tengan que competir para mantener ese estatus igualdad de oportunidades lo primero lo segundo libertad para elegir el tipo de educación

tercero gratuidad por tanto refinanciación del sistema la consejería de educación desarrolla directamente unos centros y en otros tienen

jurídicamente debiera hacer alguna matización una encomienda de gestión les encomienda que los gestionen pero no pagan la encomienda no la paga suficientemente entonces si pedimos gratuidad tenemos que pedir financiación justa

ahí vamos a estar totalmente de acuerdo hemos llegado a la época de la educación específica el niño de altas capacidades el niño que viene de otros países y no sabe ni euskera ni castellano el niño que tiene dislexia

el niño que tiene cualquier dificultad socioeconómica

es la época de la educación de la especificidad y además les voy a decir una cosa

lo que está pasando con la demografía es tristísimo pero nos da la

de ya que vamos a tener menos niños podamos atender a la especificidad mejor siguiente punto excelencia señores que es que da un poco de lacha decirlo pero vamos fatal

el último me dirá la consejera

es el sitio donde hay menos abandono escolar claro si bajamos mucho el nivel

por las evaluaciones internas que estamos haciendo que yo porque intento ser educada a la persona que nos lo expuso que hablaba de estabilidad le dije sí sí estabilidad pero afortunadamente la persona de elkarrekin podemos que estaba allí

estabilidad no estancamiento estancamiento estamos estancados tenemos que perseguir la excelencia

que me van a decir ustedes que es menor pero para nosotros no es menor porque es la herramienta para funcionar en el mundo extender y garantizar el aprendizaje del inglés señora ubera ahí podremos coincidir en muchas cosas

primero en una ponencia viene mucha gente a dar testimonio

informarnos y eso lo podemos hacer perfectamente en la comisión de educación perfectamente podemos llamar a todo el mundo que quiera que creamos

y luego el momento de esa discusión que desde luego es necesaria

de educación es que aquí lo que falta es que nos presenten la ley de educación entonces nos reuniremos entonces

sobre lo que pensamos lo que querríamos añadir lo que querríamos quitar

ese va a ser el momento el momento en que consideraremos la ley de educación y quiero recordar que en el calendario está para dos mil diecinueve la verdad un poco preocupada sí que estoy porque si se dan ustedes cuenta

del primer trimestre en el segundo trimestre a parte de tener el periodo vacacional de la semana santa y pascua vamos a tener otros quince días de

porque tenemos una campaña electoral nos presentamos en junio julio y agosto y la mitad de septiembre todos sabemos cómo vamos y entonces entero nos queda el tercer trimestre le aseguro que nosotros estamos preocupados por cómo va el calendario ahora

después de que todos nos conocemos bien unos a otros después de que todos podemos llevar a la comisión de educación a todo el mundo que creamos que puede aportar algo ese debate que usted dice ese debate nosotros pensamos que tiene que tener lugar cuando tengamos un texto

gracias presidenta bien yo no me voy a sentir ni molesto ni indignado ni mucho menos por las referencias que ha hecho la señora bengoechea

creo que es más que evidente que todo el mundo sabe que el modelo educativo del partido socialista y el del partido popular son divergentes sin más

que nos trae euskal herria bildu yo le quiero agradecer a la señora ubera el tono y la actitud a veces casi evangélica y angelical con la que nos ha planteado el tema pero quiero decirle que hay veces parece que se olvidan algo

usted lo nombraba antes hace no tantos meses ya debatimos sobre este tema sobre el documento de acuerdo de bases para la educación debatimos este documento en un debate monográfico en la comisión de educación para sentar esas bases para una futura ley de educación

entre los grupos que quisieron participar en la mejora del texto los que quisimos formar parte de él y aportar algo en común entre todos

y se limitaron a defender desde el primer minuto la devolución del documento

para trabajar sobre la materia que ustedes no trabajaron en su día en aquel pleno monográfico eso es la realidad señora ubera nosotros podemos entender

y que incluso algunas compartimos pero si llegamos a un común todos los grupos parlamentarios algunas cosas había y era que era un documento muy genérico es verdad que existían elementos positivos pero que había elementos que faltaban

para hacer las aportaciones pertinentes pero desde luego lo que de principio a fin no compartimos fue ese criterio de anulación y de evolución del texto

hasta ese momento y en eso no estábamos de acuerdo nos pareció que era un momento bueno para poder mejorar el documento elaborado en primera instancia por el departamento para introducir novedades o precisiones que nos pudieran parecer interesantes o novedosas

que con sus defectos hay que valorarlo y que ustedes no lo quisieron valorar ni votar ni participar en la votación

en su idea y tenemos la convicción de que es necesario lo hemos dicho muchas veces un acuerdo para la futura ley de educación que establezca las medidas necesarias para mejorar la educación en todos sus ámbitos y que sean de obligado cumplimiento y no sujetos a vaivenes políticos en eso estamos de acuerdo y supongo

por tanto seguimos defendiendo el actual marco competencial y las posibilidades que nuestro

que encaje dentro del marco competencial y que mejore todo aquello que sea preciso porque tiene un amplio margen de mejora

en primer lugar hablábamos de la escuela pública como el eje central del sistema educativo

se hablaba también de impulsar un modelo de educación integral que se adecue a la ciudadanía del siglo veintiuno con objetivos estratégicos europeos del dos mil veinte de una educación pública laica pública equitativa integradora de calidad inclusiva y científica una educación que potencie la promoción del talento no debemos olvidar que nuestro sistema educativo goza de una gran financiación y por ello debemos de ser capaces de invertir los recursos de forma más eficiente

y para obtener ese rendimiento se establece dotarles de estabilidad a los equipos docentes reduciendo la tasa de interinidad y mejorando la tasa de continuidad del profesorado de cada centro además de establecer medidas para crear un profesorado bien formado y competente si queremos alcanzar la excelencia para ello se apuesta y se recogía

las ofertas públicas de empleo con carácter anual como método de conseguir la estabilidad del profesorado trabajar en la tasa de inmigración que sobre todo en estos momentos soporta la escuela pública

a una creciente segregación del alumnado que es evidente comparando las dos redes y garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos mediante el desarrollo de programas de calidad de todo eso se hablaba en las propuestas de resolución

a la que nuestro grupo siempre ha prestado un especial interés generalizando un sistema educativo

ante los avances internacionales pensamos que el nivel de inglés hoy en día no es suficiente parece evidente y está resultando cada vez más necesario en un mundo globalizado donde muchas de las competencias se evalúan en el conocimiento de ese idioma y que las tres lenguas deben ser herramientas en el proceso de aprendizaje

a partir del cuarto curso de educación primaria en todos los centros educativos y se sientan las bases para que los centros educativos

y el desarrollo integral de la persona poniendo en valor el rechazo a toda forma de discriminación

las resoluciones aprobadas son con las que mi grupo trabajó para tratar de definir ese marco común

pero lo que no puedo entender es que se nieguen siquiera a participar ni en la votación de las enmiendas y que se limitaran desde la comisión anterior hasta ese pleno monográfico en pedir la devolución del texto todo su argumento de fondo y a nosotros nos parece que eso

es evadirse como hicieron aquí el otro día cuando había que votar

lo que viene a hacer es una abstención y no otra cosa en cualquier caso nos hubiera parecido importante y necesario

creo que es de valorar por todo lo que he citado en mi intervención aquel trabajo y por ello mi grupo va a votar en contra de su proposición de ley eskerrik asko

de una futura ley de educación hablamos en nuestra opinión también

de educación hablamos de no repetir ese proceso iniciado por el departamento de educación para ese documento de bases porque era un proceso

pero que nosotros lo pusimos en cuestionamiento desde el primer momento no porque nosotros y nosotras solo lo hiciéramos muchísimos agentes educativos lo ponían y ya si desde el primer momento hay agentes educativos

que los resultados no van a ser lo suficientemente motivantes para hacer una ley en condiciones y a día de hoy lo que tenemos se ha dicho ya

y el partido popular un documento de bases totalmente insuficiente un documento de bases que

no por esta iniciativa que estamos debatiendo en estos momentos sino por todos los agentes de la enseñanza pública en

y nosotros seguimos además con las mismas dudas que teníamos ese veintidós de octubre zertarako lege berri bat zein zen eta zein da

de no repetir el proceso iniciado por el gobierno lo décimos como lo dijimos en esa comisión fue un proceso participativo en parte pero diseñado dirigido

en cómo había que hacer el proceso y luego ya ponerse a debatir el documento

y guionizado y lo vuelvo a decir dejó fuera

participar del propio diseño del proceso de debate de ese acuerdo de bases y curiosamente son los agentes de la educación y la enseñanza pública los que dejó fuera no

fuera y creo que como empezó mal ese proceso y nosotros alertamos de ello acabó mal ese debate en la comisión de educación porque tener

la mejor de las soluciones por mucho que evidentemente legalmente saliera adelante pero porque ya llegó incluso en el consejo escolar de euskadi tenemos que analizar los votos particulares que se hicieron en el dictamen que aparte de que no sea vinculante

en la comisión de educación qué decían esos votos particulares y de quién eran y cuánto peso representan esos votos particulares si ponemos a medir

que son los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras de la enseñanza que son las familias de la escuela pública cuánto peso tiene eso en un debate sobre educación

beste dokumentu batzuk edo beste adostasun batzuk tenemos nuestras propuestas evidentemente las presentamos aunque luego solo se votaran las tres o cuatro primeras en las que pedíamos la devolución de ese documento pensamos que

la futura ley de educación si entre todos y todas decidimos además que esa futura ley es necesaria

berriak un sistema educativo que se construya sobre bases

al fenómeno de la segregación escolar por razones de clase y por razones de origen que

último sea la formación integral de la persona y no la mera empleabilidad para sostener el sistema productivo y además medidas de urgencia que creo que tenemos que tomar

bueno vamos a ver señora ubera mire que yo y todo nuestro grupo intenta

no ese consenso pero por lo menos ese buen trato que debiéramos tener todos en común

hemos sido elegidos por los ciudadanos para representar a todos a ver le voy a decir una cosa sacamos trapos sucios

grupo porque le voy a decir una cosa los miembros de mi grupo como

y los miembros de otros colectivos hemos estado dispuestos a dar la vida por este país cosa que otros no han estado así es que por favor un respeto y eso se lo voy a exigir un respeto porque yo

por este país y eso me lo llevaré hasta el final y la verdad es que siento tener que decirlo

porque todos pero por este país yo he estado dispuesta a dar mi vida

me convierte en un diablo a ustedes les convierte en habitantes del inframundo

o sea que por favor un respeto dicho esto el diagnóstico el diagnóstico vamos a ver los diagnósticos señoras y señores compañeros y compañeras los tenemos hechos

están hechos porque si hay algo que tenemos en educación son

continuas y constantes creo que en la última evaluación que se tenía que hacer ahora ha habido algún problema de adjudicación de la empresa y se van a retrasar las noticias que he tenido pero tenemos evaluaciones constantes técnicas lo que no tenemos son

pronósticos cada uno tiene un pronóstico diferente y cada uno de nosotros cada grupo tiene unos tratamientos unos medios pero no me hablen de diagnóstico compartido si es que un diagnóstico en educación a no ser que estemos hablando de algo emocional o de algo ideológico

está hecho y ahí le tengo que decir a la representante del pnv que la verdad tiene un optimismo a prueba de bombas

que es un sistema que goza de muy buena salud que el norte

pero que lo tienen claro que no sé qué mire si tienen claro el norte pues creo que enfrente el barco tiene muchas

muchos bajíos muchos escollos y eso es así no porque lo diga yo que soy ceniza sino eso es así porque los diagnósticos que tenemos nos lo dicen no es un sistema que goce de salud no es un sistema que esté llegando a las metas que todos deseamos y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo y quizás ahora yo sea ingenua pero yo pongo mucha esperanza en la nueva ley de educación porque esperanza en ella y la estoy esperando pero por favor ya le digo

a una catarata o algo así poco más tenemos que añadir creo que todo está dicho hemos hablado ya de cuáles son nuestros objetivos

hemos hablado ya de que estamos abiertos a y a compartir y a consensuar con todos porque seremos el diablo pero ya les digo más abajo de nosotros está el inframundo eso que quede bien claro y nada hasta cuando ustedes quieran señora ubera

y creo que no hace falta hacer aquí una competición de quién defiende más en eso seguramente

una competición y quien lo dice más seguramente sean ustedes pero quien defiende más y mejor

los intereses de los vascos y de las vascas pero yo creo que eso hay que tener en cuenta con quién se tiene también el acuerdo de base de educación es con el partido popular el mismo que ustedes están criticando que va en contra de las

la escuela aquí en euskadi y sobre el papel de la comunidad

hori martxan jartzeko para hacer un debate serio sosegado dejar también

algunas de nuestras propuestas de máximos

si es por la priorización de la red pública y por un sistema educativo inclusivo nosotros y nosotras lo vuelvo a decir seguimos dispuestos y dispuestas a llevar a cabo ese debate

arratsaldean benetan erresuminduta con el permiso de los portavoces del debate sobre la remolacha

por un día podemos incrementar la dosis diaria recomendada de azúcar a ver si encauzamos esto un poco mejor lehen

febrero calor sol falta de nieve falta de frio es más hemos comido a la sombra hoy en la calle quiere decir que la crisis de los pinos no solamente no está parada sino que va a más

estamos ante una crisis provocada por la enfermedad de la banda roja o marrón como quieran

que no solo está afectando al propio sector sino que de forma directa y lógica también está poniendo en duda

durante las últimas décadas en los montes una crisis que debe suponer un antes y un después nosotros así lo entendemos en la gestión de los montes

para debatir una política nueva agroforestal que queremos y además que la necesitamos hoy euskal herria bildu creo que todos los grupos lo tienen claro viene en modo propositivo veremos a ver si lo conseguimos al final de la tarde pero entendemos que el modelo forestal que tenemos

y por las diferentes diputaciones desde luego a fracasado con enfermedad o sin ella con un cultivo masivo de pinos o sin él la realidad una vez más nos recoloca y nos da

alternatibak eta soluzioak bilatzeko asmoz otra motivación para poner eta pnl hoy aquí es poner en cuestión la gestión agroforestal que nos hasta aquí

araba con una gestión pública mayoritariamente con entidades locales como garantes de sus montes con un aprovechamiento sostenible y sin un fin lucrativo pues es lo que tenemos

un ejemplo de cómo con el consenso con la participación diversificación con el trabajo de las diferentes entidades y las administraciones

lógica y unida el desarrollo local y cómo no al equilibrio territorial

gestión mayoritariamente privada y cada vez más lejos de la actividad agroganadera

han estado unidos siempre al sector primario vasco han sido históricamente la renta complementaria para quienes vivían en el sector primario que pocas alegrías daba pocas alegrías da hoy

paralela eran una inversión segura los pinos pero esta crisis ha dado con la que la inversión ha dejado de ser una inversión y es un gasto los pinares ya no están hoy unidos al sector el tanto por cien es ínfimo

buscando únicamente la rentabilidad económica incluso hay pinares heredados que se heredan que supone una carga inasumible para aquellos que no han vivido la gestión

socioeconómicos sino también medioambientales un debate público repito como garantía de transparencia y de participación y una garantía de hacer política en mayúsculas y de escuchar no solamente a los propietarios

diría que colateral pero prácticamente directa también tiene cosas que decir y a todos los agentes que entendemos tengan interés en este tema

que un recurso productivo son un recurso social y un recurso medioambiental pero hoy nos trae aquí la enfermedad de los pinos ante esta enfermedad que no es nueva viene de muy atrás poner

pero es que tampoco se han tomado medidas preventivas bi mila hamalauan gipuzkoako foru aldundia gure esku zegoenean

más allá que ser paliativa es estructural tiene cuatro pasos muy sencillos y entendemos que no estar de acuerdo es tener un poco las luces en corto en vez de poner las luces largas tiene cuatro puntos diagnóstico compartido repito

debate abierto porque es que tiene que ser así planificación mirando hacia futuro a medio y largo plazo y desde luego el plan de desarrollo rural que como garante que es de recoger el dinero que viene de europa

hay que gestionarlo para que nos pueda servir nuestra proposición no de ley era lo suficientemente abierta para haber podido llegar a un acuerdo entendemos pero bueno

entenderíamos como algo lógico un acuerdo entre los partidos como un acuerdo de país parece que no se va a dar pero yo creo que se lo debemos a la sociedad entenderíamos que podríamos buscar un acuerdo de mínimos sí pero no cualquier acuerdo

es que hay que hacer otra política forestal no es que queramos es que esta nos ha traído hoy aquí un acuerdo donde se plantee un debate abierto porque no se tiene que tener miedo a debates abiertos y con agentes diversos es nuestra responsabilidad además hacerlo así

y sobre todo que tenga en cuenta efectos socioeconómicos pero medioambientales y un acuerdo donde las ayudas del plan de desarrollo rural sirvan de base para abrir oportunidades

planteamos abrir una línea en el plan de desarrollo con ayudas para servicios agroambientales o ambientales bueno que cuidar los montes también tenga su recompensa por qué no no hoy lo que va a salir de este debate desde luego es un acuerdo de mínimos acabo de ver ahora la transacción es un acuerdo de mínimos es algo casi que ya se está haciendo entonces no es que estemos perdiendo el tiempo a estas horas aquí pero sí que da la sensación de que está un poco caducado

absolutamente claro pero ni siquiera se pone en duda lo que ha pasado hasta ahora yo creo

no se puede dejar la gestión y el debate solo en manos de quienes tienen intereses de forma directa porque saldría condicionado a su beneficio saldría un poco escorado en cuanto a la fumigación bueno lo acabo de decir sí vale

no voy a entrar a la fumigación como tal porque qué hacemos para frenar efectivamente hay que dar soluciones pero es la fumigación la solución es la pregunta

en prácticamente verano y estamos en febrero hay garantías se va a fumigar sin contaminar hay garantías de que no vamos a contaminar ni acuíferos ni nada hay garantías

no tenemos las autorizaciones tampoco qué haremos si los propietarios ayuntamientos entidades locales se oponen a fumigar qué hacemos pasamos por encima con las avionetas y seguimos bueno o es una cuestión de decir que hay solución sabiendo que no lo es o asumimos que fumigar no sirve

no sé si que fumigue o no pero por lo menos que no vendan humo y que si tiene que fumigar que lo haga con todo las garantías

desde euskal herria bildu planteamos que tiene que haber criterios técnicos ni siquiera políticos si todo dice que es así

por encima de posicionamientos políticos nosotros nos quedamos al margen y a la espera

sostenible y respetuosa pero respetuosa con todo con las personas con los ríos con el medioambiente en definitiva

si vienen propuestas caducadas no vamos a estar esperando eskerrik asko eskerrik asko

prudencia esa sería la palabra que definiría nuestra postura a día de hoy frente a las fumigaciones necesitamos que el gobierno con prudencia con responsabilidad con prudencia y responsabilidad porque estamos ante un problema complejo un problema muy complejo y por lo tanto las respuestas tienen que ser lógicamente complejas no podemos decir tenemos una enfermedad en unos cuantos pinos vamos a fumigarlos porque tenemos

hectáreas de pinos enfermas tolosaldea urola deba bidasoaldea durangaldea tenemos un montón de hectáreas de pinos enfermos y tenemos una propuesta encima de la mesa por parte del gobierno de fumigar con avioneta y con un producto que en dos mil quince ya

por lo tanto tenemos una posibilidad de efectos de impactos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas la propia agencia de seguridad alimentaria en su informe oficial que es el único que a día de hoy nos ha remitido el gobierno ya lo mostré hace dos viernes establece

supone un alto riesgo para pájaros para mamíferos

y para organismos que viven en el suelo es decir es un alto riesgo para la práctica totalidad de los seres vivos y yo imagino que eso incluye

como digo el producto que se plantea utilizar en la fumigación

hasta el dos mil veinticinco pero es un producto que ya está en cuestión y como digo no se van a fumigar dos ni tres ni cinco hectáreas sino que se pretenden fumigar

hectáreas y es cierto que nuestros

pero en general nuestros montes tampoco están nada bien y el sector maderero tampoco está nada bien y por lo tanto por lo tanto ante un problema complejo tenemos que actuar de una forma compleja eta arazo honi aurre egiteko

aurrean jabeak lasaitzeko ez da irtenbide onena la respuesta a un problema complejo como digo muy bien planificada en la transacción a la que han llegado los grupos que soportan al gobierno con el partido popular hay tres puntos

y en los tres hablan de diseñar una estrategia de futuro vaya vaya

esa estrategia de futuro se presentó en octubre del año pasado se llamaba estrategia vasca para la recuperación de los bosques de coníferas y según

con tres ámbitos de actuación generación de conocimiento en torno a la enfermedad

cómo puede haber una transacción pidiendo una estrategia hoy si tenemos una estrategia hecha pública en octubre de dos mil dieciocho

tal estrategia no existe nadie ha podido ver ningún documento de esa estrategia no se publicó ni se aprobó en el consejo de gobierno no ha habido ningún trámite oficial incluidos los informes

que debería haber tenido no ha sido no ha pasado por el trámite de evaluación de impacto ambiental como todos los planes estratégicos deberían de pasar no hay tal estrategia

improvisada y yo diría también que irresponsable valga

la nota la respuesta que dio a este parlamentario el departamento de medio ambiente cuando le preguntamos a ver si tenía conocimiento de la estrategia y si tenía conocimiento de los planes para fumigar cuarenta mil hectáreas de pinos la respuesta el veintinueve de noviembre es decir un mes después de que se hubiera publicado supuestamente la estrategia es este departamento no dispone en estos momentos de información detallada respecto al eventual plan de aplicación del óxido cuproso mediante fumigación esto fue ni más ni menos lo que dijo el departamento de medio ambiente

por lo tanto no tenemos ninguna planificación y ya lo ha dicho la señora lopez de arroyabe estamos poniendo en riesgo

más riqueza que lo que son los pinos nuestros montes no solamente tienen pinos no solamente tienen madera también tienen madera la madera tiene su valor evidentemente

hay arroyos hay fuentes hay hongos hay setas hay plantas hay animales que comen de esas plantas animales domésticos hay caseríos

hay aves hay animales hay seres vivos también tienen un valor también tienen un valor un valor económico vamos a poner en riesgo

porque tengamos en cuenta que esta es una enfermedad crónica el hongo de la banda marrón y el hongo de la banda roja son enfermedades crónicas de nuestros pinares

se están tratando desde hace mucho tiempo y con una efectividad limitada

nuestro grupo parlamentario tiene claro que ante un problema complejo como este la falta de prudencia la falta de reflexión la falta de una planificación lastra definitivamente cualquier respuesta y sin esa respuesta nuestro grupo desde luego

hectáreas de pinos sin saber ni qué efecto va a tener eso sobre la enfermedad ni sobre la salud de las personas

buenas tardes gracias señora presidenta señorías señor consejero efectivamente nuestros bosques están enfermos muy enfermos el sector forestal del país vasco se sustenta principalmente en el pino insignis o radiata sector que da trabajo a veinte mil personas en el país vasco

la banda marrón la banda roja como se conoce esta enfermedad de los hongos

a percibir síntomas potentes de esta enfermedad en gipuzkoa lo detectaron en el dos mil catorce según nos han dicho y los primeros análisis hace un año se encontraron en bizkaia mil cien hectáreas afectadas a los seis meses ya eran dieciséis mil hectáreas las afectadas de las

por lo tanto esto nos da una idea de la virulencia y del recorrido tan intenso que ha tenido esta enfermedad

pero es en el último año cuando se ha generado las condiciones especiales precipitaciones abundantes y más calor

y adquiera dimensiones nunca vistas algunos ingenieros

afectados por la virulencia de estos hongos no solo el sector todos los vascos

y el efecto visual es tremendo parece que nos están llorando los pinos y apelando a hacer algo yo no considero que las instituciones no han hecho lo que debían que todos nos hemos visto sobrepasados por la situación desde el sector administraciones diputaciones expertos ingenieros forestales

en el dos mil catorce eh bildu gobernando en la diputación de gipuzkoa

la enfermedad y qué hicieron pasaron la patata

pero no estamos en que diputación es competente qué hizo la diputación nada nada pasarle al siguiente eslabón el papel por lo tanto creo que esta situación

ha sobrepasado y son los propios ingenieros forestales los que admiten esta situación y yo me fio de ellos son los técnicos conocedores

y desde luego me fio creo que no es momento de criticar señor becerra es momento de arrimar el hombro y ver qué podemos hacer hay quienes aprovechan cualquier momento de debilidad para azotar al sector agrario forestal esto es un lujo que algunos se permiten

por eso se lo permiten por qué sabe lo que ha costado llegar hasta aquí

no se puede sacar el látigo y dar así porque sí porque se me ocurre y me parece un sector suficientemente débil para darle con otros sectores no hacen eso señorías vale de eslogan de pancartas para ejercer eso que les gusta tanto prohibir cómo les gusta prohibir ustedes los de la izquierda prohibiendo todo el día déjennos

y actuar con responsabilidad y que también la ciencia del conocimiento se pueda aplicar

de sus percepciones o sus supuestos conocimientos prohibir y además añadir ácido a la herida por si acaso mire el sector forestal del país vasco además de contar con veinte mil empleos directos

muchas navales juntas muchas muchas eh y no le importan a usted nada pero nada

gestiona el cincuenta por ciento de la superficie del territorio de la comunidad autónoma vasca el cincuenta por ciento de la superficie y además esto además de generar empleo y beneficios económicos genera beneficios medioambientales y genera beneficios sociales

a fijar la población en el territorio rural entonces hable de todo el arco porque es más que una actividad económica

palpable no hay que recordar que el monte la madera en el siglo diecinueve y anteriores era un recurso al que no solo miraba el sector primario

se necesitaba madera madera cantidad de madera esto llevó a que muchas hectáreas de terreno estuvieran desforestadas

hay alguien que dijo un técnico de aquel momento que dijo

madera de crecimiento más rápido era un nuevo modelo de gestión un nuevo modelo de

acorde con la necesidad no estaban pensando en lo que iba a pasar ahora a finales del siglo veinte o principio del siglo veintiuno y trajo el pino y efectivamente porque

pero luego cambió y el pino se ha quedado ahí y ahora está enfermo

ni la variedad ni la variedad ni el sector y eso es lo que no vamos a consentir que se estigmatice el sector que creo que no

no es cuestión de tirar por tierra lo que durante más de cien años ha contribuido al desarrollo económico del sector forestal y también al medio ambiente

esto nos debe de hacer trabajar en cómo fortalecer y mejorar la gestión forestal sostenible de los bosques cómo transmitimos lo que nos aporta a la sociedad los bosques sanos y productivos para evitar que nos abandone hacer

investigar para conseguir métodos sostenibles para tratar las enfermedades de la madera y con esto quiero insistir en que no vale alarmar a la sociedad y poner el grito en el cielo porque se esté estudiando que se ha pedido un permiso porque para ensayar hace falta un permiso

alarmando de que hay componentes químicos que se va a fumigar

cuando nadie ha decidido que eso se va a hacer se está investigando por lo tanto por qué alarmar gratuitamente por qué

suprimido más de un ochenta por ciento de fitosanitarios el cobre está ahora en cuestión pero está

está autorizado hasta el dos mil veinticinco de momento no está prohibido

usted exige o se erige

para los problemas que afectan a la sociedad vasca en este caso y señor becerra

son ninguna solución única para nada no son la solución única para nada no sé si se han dado cuenta

forzada de argumentos para oponerse forzada porque usted sí que sabe que hay una estrategia que no ha pasado qué que no ha estado por nada usted ha dado aquí

o sea de qué me está hablando le vale una cosa y la contraria según de que rama cojee la iniciativa

y no veo ni un signo de un modelo nuevo de gestión no veo ni un solo signo no hace ni una sola mención

ustedes lo anuncian pero no sabemos a qué se refieren ustedes con lo cual les vale para todo les vale para la remolacha les vale para esto no vamos a ver

y de eso podremos valorar porque si yo veo su iniciativa dice preocupación

la que tenemos todos la misma preocupación que tenemos todos revisar los modelos de gestión forestal también lo pedimos revisar los modelos de gestión forestal coordinar búsqueda de soluciones claro

que es preocupación cualquier tratamiento que se haga los efectos que puede tener para la población y para la salud claro por eso pedimos que se investigue pero hay que valorar todo efectivamente y luego

que autorice la fumigación yo es que no yo no sé si se va

y desde luego para investigar necesitan autorización para investigar necesitan la autorización otra cosa es que en base a un trabajo de expertos se decida que hay que fumigar no lo sé yo esperaré a ver cuál es el resultado de la investigación y después podremos opinar

permítame que me presenten un informe de lo que se ha evaluado para

de antemano negar cualquier evidencia científica que pueda venir me parece

presidenta señorías creo que hay algunas notas de este debate que son absolutamente

la segunda que esa enfermedad se propaga a una velocidad tremenda y la tercera que o se interviene o

cada día que pase yo creo que desde esa perspectiva es desde la que algunos por lo menos enfocamos la necesidad de un tratamiento

que usar óxido cuproso para el pino significa que van a morir

que se van a contaminar las aguas que nos vamos a envenenar que va a desaparecer la naturaleza que el medio ambiente va a quedar

para el futuro pues desde luego yo creo que lo que hay que hacer es intervenir para

yo creo que la propuesta que tendríamos que hacer y además por unanimidad es

y que no aparezca por ningún lado por lo tanto si hablamos del óxido cuproso

si se utiliza dónde se utiliza quiénes lo han utilizado qué ensayos se han hecho

y parece que las cosas no van por ahí pero en cualquier caso quiero dejar mi responsabilidad fuera de cualquier intervención contra la civilización

estaríamos ante un gobierno absolutamente irresponsable ante unos técnicos con un instinto asesino incalculable y ante una situación

de tratar en fin espero que las cosas no vayan por ahí hasta donde yo sé este es un tratamiento

en las dosis adecuadas ha generado sus efectos

no ha contaminado aguas no ha creado problemas colaterales y por lo tanto creo que esa parte es una parte científica es una parte técnica que debe de gozar de todas garantías por supuesto de todas las que son posibles como en tantas cosas de la vida hay muchas cosas que no nos cuestionamos cada día y que sin embargo no tienen garantías de éxito podría hablar de la sanidad o podría hablar de muchas más cosas

la garantía de solución de la enfermedad ni que uno vaya a vivir interminablemente entonces bueno no hay garantías siempre en los tratamientos

a veces hay que ir analizándolos a medida que se van produciendo pero creo que estamos ante una propuesta que tiene su sentido que tiene su razón que tiene su experiencia

está planteada en unos términos muy por debajo pero muy por debajo de los niveles autorizados para el tratamiento con este tipo de producto

es cierto que al ritmo que avanza la propagación de esta enfermedad en el pino no parece que queda

hay la mitad de la masa forestal de gipuzkoa infectada si hay casi

y ya ha empezado a tener una determinada notoriedad aunque esté muy por debajo todavía

la alavesa yo espero que los debates parlamentarios los debates de expertos y los debates de gobiernos no signifiquen tal dilación de una atención y una solución al problema

totalmente irreparable y que solo quede la tala de toda la masa forestal porque

todos los pinos bueno yo creo que hay que hacer el debate con una determinada ponderación y que la propuesta que se plantea va en ese sentido la enmienda transaccional que hemos

obviamente cuando una masa forestal se pone en riesgo en unas proporciones tan altas parece que

que hay que ver hasta dónde podemos llegar con los nuevos fenómenos atmosféricos con las nuevas situaciones de cómo afecta la climatología

razonable lo más acertado a futuro o si tenemos que ir pensando en alternativas a mí me parece que ese debate está bien correcto que hay que hacerlo pero yo creo que

si se une con el problema inmediato me parece un error porque el inmediato avanza a una velocidad extraordinaria y sin embargo el de medio y largo plazo obviamente como su mismo nombre indica tiene

a los que el corto no puede esperar yo creo que la responsabilidad del gobierno vasco

de las diputaciones forales que son las competentes en esta materia de los expertos sumar aunar criterios y buscar la mejor solución creo que esta es la que han propuesto en cualquier coso todavía habrá que hacer

se considere que esa es la intervención ensayos y ver también

sí estamos en la alarma frente al problema del pino

en relación a toda las cosas que aquí se han soltado creo que con bastante

eztabaidatzea bien para empezar ya que ahora no está el consejero de salud como se le echa la culpa de casi todo ni de la enfermedad de la banda marrón y de la banda roja es responsable

de la patología que me está machacando y que me ha dejado reducida mis capacidades ya escasas intelectuales o sea que intentaré hacer lo que pueda

de lo que tratamos hoy es de que algún grupo parlamentario parece toda la política forestal que viene realizándose desde hace muchos años en euskadi al hilo de una patología o dos que afectan seriamente a una especie forestal concreto

todo ello desde un mensaje reiterado hasta la saciedad el monte vasco es un monocultivo de pino radiata

en euskadi la superficie arbolada es del cincuenta y cinco por ciento que ya es

y el cuarenta y ocho por ciento bosques naturales es decir según el inventario forestal último el del dos mil dieciséis tenemos un monte equilibrado entre coníferas

a alguien no le parezca bien y está en su derecho porque las opiniones son volátiles pero los datos son tozudos a partir de estos datos globales podemos ponernos a debatir lo del monocultivo resultando que la especie mayoritaria el pino radiata ocupa el sesenta y siete por ciento de la superficie ocupada por coníferas

que se pueda hablar estrictamente de monocultivo aunque yo podría transaccionar por la de cultivo mayoritario entre las coníferas pues en el montante total de la superficie arbolada de euskadi el pino insignis representa el treinta por ciento que ya es pero de

va un mundo porque por cierto el haya ocupa cincuenta mil hectáreas y a nadie se le ha ocurrido hablar del monocultivo del haya

nolatan solo les daré unos pocos datos en bizkaia el cuarenta y uno por ciento de las explotaciones forestales

de hecho el pino radiata supuso la salvación de no pocos caseríos en euskadi y por tanto del posible mantenimiento de una superficie agraria que hubiera desaparecido en conclusión euskadi tiene un monte diverso donde la frondosa supera en superficie a la conífera donde el pino radiata es la especie mayoritaria y donde la propiedad está tan propiedad como la pedrea al tiempo

disfrutar de superficies protegidas como la red natura dos mil de euskadi ciento uno mil hectáreas arboladas de las cuales el veintiuno por ciento con coníferas y el setenta y nueve por ciento

que tenemos esa relevante superficie protegida tenemos una superficie forestal con vocación

según además el libro blanco de la madera de euskadi se genera

no voy a darles más datos porque entiendo que la foto ya ha quedado establecida este resultado no es algo azaroso aunque evidentemente cada propietario

en función de su manera de ver las cosas y así puede que alguien prefiera tener cerca de casa un bosque que le atraiga por aspectos románticos estéticos

o alguien pueda preferir sacarle más rápido retorno económico y que su hijo cuando ya sea mayor

si analizan los decretos de ayuda de las tres diputaciones podrán observar

hay un diferencial de ayuda de entre el treinta y ocho y el cuarenta y cinco por ciento en función de que se quiera plantar o hacer distintas

en conclusión tenemos una historia de panorama forestal de más de cien años

de política forestal tomadas por las diputaciones incluido un plan forestal aprobado en esta misma cámara por unanimidad en junio de mil novecientos noventa y cuatro que preveía de una duración hasta dos mil treinta es decir hoy todavía está vigente ese plan forestal nos han traído todo eso a la actual situación

es una situación forestal equilibrada entre bosque productor y bosque protector entre monte autóctono y cultivos forestales produciéndose al mismo tiempo riqueza económica y riqueza biodiversa ambiental solo

verá que hay una denominación que se repite mucho la de bosque mixto atlántico

que esa denominación no deja de ser en gran parte de esa superficie un eufemismo de lo que sería monte abandonado convertido en zarzal dejado a sí mismo y que efectivamente es una zona con enorme biodiversidad eso es cierto

de foco de incendios y se trata de una superficie que hay que abordar con urgencia izan ere

vamos a la patología que ha provocado las iras de quienes plantean que todo se debe a la política forestal impulsada por las administraciones miren es cierto que hay un cultivo importante de una especie que ya lo hemos dicho el pino y por tanto si surge una patología

es que se extienda más rápido que si hubiera solo unos pocos pinos no sé

no hubiera tenido relevancia si la remolacha no hubiera estado toda juntita para que fuera más eficiente la cosecha

si no hubiera habido olmos ninguno hubiera muerto por la grafiosis que por cierto acabó con prácticamente todos sin que nadie

incluso le voy a decir más un ejemplo más próximo si los niños no fueran a la guardería

es una cuestión de concentración si llevamos más de cien años con una superficie de pino

y aun habiendo sufrido otras patologías porque se trata de un cultivo forestal pero cultivo

en una patología en vez de perdernos en ese debate lo que debemos hacer primero es buscar soluciones al asunto sin quedarnos mirando el dedo y entendemos que una vez diseñado un diagnóstico conjunto de las administraciones

para empezar la eliminación o minimización de la patología porque seguramente tendremos que vivir toda la vida con ello

tema muy importante una retirada ordenada de las masas más afectadas de manera que esa retirada afecte lo menos posible al mercado y al precio de la madera y respecto a la aplicación de medidas de eliminación de la enfermedad entendemos que el cobre es un sistema que en otros lugares como chile o nueva zelanda

no obstante entendemos que se debe investigar y ensayar en superficies amplias para comprobar su eficacia aquí al tiempo de analizar su posible impacto ambiental y en la salud de las personas

la agricultura ecológica en mucha mayor concentración que la prevista en su caso para el pino y como último paso las administraciones competentes en la materia las diputaciones forales conjuntamente con el sector deben ponerse a trabajar para el diseño de políticas de futuro

para seguir construyendo un monte vasco en el que convivan coníferas frondosas

es decir economía forestal economía rural y biodiversidad

y no se nos pase que sí observamos la superficie creciente del eufemístico bosque atlántico o bosque abandonado el problema más grave al que nos vamos a enfrentar en un futuro próximo es el que no se sigan plantando árboles en nuestros montes y no olviden que como dice un proverbio japonés mil árboles que crecen hacen menos ruido

es tarde pero no me puedo resistir a hacer la réplica señora lópez de ocariz

no ha leído la mía porque yo no hablo para nada en mi iniciativa ni de fumigar ni de nada hablo de cuatro cosas de hacer un diagnóstico entre los agentes

porque una planificación que se pueda hacer en mil novecientos cincuenta está muy bien en el mil novecientos noventa y tantos también

hay que hacer una planificación y la puesta en marcha del pdr efectivamente

es que aquí están hablando de años y estamos hablando del año mil ochocientos ha pasado un siglo

que lo hicieran mal señores señoras de eh bildu estuvieron en la diputación y lo hicieron muy mal pues le voy a dar un dato señora lópez de ocariz

informe se hizo el veintiocho de enero de dos mil quince se pidió una reunión aquí en gasteiz en el gobierno el tres de febrero del dos mil quince y creo que en el dos mil quince dejamos de gobernar han pasado cuatro años creo que ya es tiempo de que cada uno asuma sus responsabilidades a mí me da un poco la risa porque para cuatro años que estuvimos parece un siglo eso sí que parece un siglo y al pp

estamos aquí porque nos preocupa señor prieto pero señor tellería también nos preocupa porque si no no estaríamos aquí y nos preocupa hablar un poco de forma ligera señor tellería

discúlpeme y sé que le da pena porque se habrá traído todo escrito no lo he dicho yo

aquí lo de monocultivo aquí cada uno ya vayamos cogiendo nuestras posturas otra cosa es lo que queramos plantar ha dicho hay que plantar mil árboles

vayamos a mirar a galicia vayamos a mirar a cantabria esta semana pasada a ver si cuando cruzamos

libres decisiones de los propietarios efectivamente esto es como decirle al sector primario sí si son ustedes libres de sembrar lo que quieran no no son libres porque están recibiendo ayudas

nos encontraremos con pinos decía usted abandonados efectivamente hay pinares abandonados hay montes que no se están gestionando por eso antes las diferencias

es diferente la gestión y la visión es absolutamente diferente y no podemos decir que tenemos pinos abandonados que tenemos montes sin gestionar no porque

hacia la cornisa cantábrica voy acabando no solamente estamos aquí porque nos preocupa sino estamos aquí porque estamos dispuestos a trabajar me decía la señora lópez de ocariz que no

pero a escuchar también y a proponer y a plantear pero para eso necesitamos mesas en común que las competencias son de las diputaciones efectivamente

eche balones fuera también tiene su competencia que es asesorar si no no habría una mesa en la que se reúnen las cuatro partes si no el gobierno estaría diciendo que cada diputación aunque sean de mi color haga lo que quiera

una política forestal me da igual del siglo diecinueve del veinte del veintiuno que del veintidós adecuada a los tiempos y hay unos tiempos en los que

podemos regar también a las ardillas que andan por los pinos podemos hacer todas esas cosas

estamos dispuestos a trabajar sí pero no vamos a dar carta blanca para cualquier cosa eskerrik asko

hitza es complejo responder a cosas que no he dicho pero

no he hablado de monocultivo en ningún momento de mi intervención

en ningún momento de mi intervención no he hablado

las fumigaciones aéreas las ha prohibido la unión europea señora lópez de ocariz mediante una directiva de obligado cumplimiento

al ordenamiento estatal en dos mil catorce prohibido fumigar con avionetas

el gobierno del partido popular que ha permitido fumigaciones en todo el estado español durante los últimos años

y si ahora mismo las fumigaciones con óxido cuproso no tienen todavía el permiso del ministerio es precisamente

que es que la unión europea está mirando con lupa a ver qué vamos a fumigar y cómo

antes se llamaba caldo bordelés lo utilizaba mi padre

se echaba hoja a hoja en las tomateras no en avionetas

eso es lo que está mirando la unión europea con lupa ahora mismo no soy yo quien dice que se va a prohibir

lo dirá la unión europea lo dirá el ministerio sobre la legalidad vigente

claro pero no solo para arrimarme al hombro de los ingenieros forestales por qué no hablamos de los profesionales de la medicina la academia de ciencias médicas de bilbao ha alertado de los riesgos de fumigar con óxido cuproso por qué no hablamos de los profesionales de la biología

biólogos y biólogas han alertado de los riesgos que existen

miramos al hombro de los ingenieros forestales coincido con el señor prieto en que lo que hace falta es ponderación en el debate hace falta ponderación

que los pinos no se mueren por la enfermedad reducen su rendimiento

ni siquiera es obligatorio talar los pinos por la enfermedad de la banda roja o la banda marrón

el señor tellería hay que planificar una sustitución pero no estamos hablando de la catástrofe del siglo veintiuno estamos hablando de un problema grave muy grave pero no podemos matar moscas a cañonazos

esas son las que se están pidiendo informes del departamento de salud del departamento de medio ambiente de la eficacia del tratamiento estamos hablando de un problema crónico

la enfermedad de la banda marrón se conoce hace cuarenta años igual que la de la procesionaria llevamos fumigando

treinta cuarenta años qué hemos conseguido qué hemos conseguido

hagamos ese análisis qué hemos conseguido hemos acabado con la procesionaria no

entonces vamos a aplicar la ponderación vamos a aplicar la ponderación al análisis y a la planificación vuelvo a reiterar aquí había una estrategia para la conservación de los bosques de coníferas dónde está el gobierno la vendió en octubre del dos mil dieciocho no existe ahora con la transaccional para que quieren planificar bueno bienvenido sea bienvenido sea ojalá sea en beneficio del sector

ojalá ojalá eso es lo que dice baskegur esos son los datos del sector el gobierno vasco en dos mil dieciocho dijo que el empleo directo era de cinco mil seiscientos personas y

incluidos los de la industria transformadora a día de hoy

el ocho por ciento ojalá nuestro sector primario pudiera vivir de los pinos que tienen plantados el problema es que no valen no valen dinero

uno a corto plazo las enfermedades dos que el pino no vale dinero que la madera no vale dinero

y para tranquilizarlo lo único que se hace es decir tranquilos que nosotros fumigamos pues esa no es la salida

señor becerra las enfermedades normalmente

muy pocas la gripe está aquí permanente nos vacunamos todos los años y lo que hace es mutar vale bueno pues estas enfermedades probablemente no desaparezcan están

y se está investigando y yo apoyo que se investigue y mientras tanto no estigmatizo ni a la variedad ni al sector eso es fundamental bueno pues usted aquí ha hecho todo lo contrario

pero es que su enmienda también está recogida en

primer punto pide un diagnóstico nosotros pedimos el diagnóstico impulsar un debate nosotros también hablamos en todos los puntos de diputaciones gobiernos sector para hablar de este tema cómo aprovechamos cuál puede ser el aprovechamiento forestal

un debate público pide usted y nosotros también y lo que pedimos usted dice

el plan de desarrollo rural contenga medidas tiene se pueden ampliar efectivamente

en su iniciativa no hay un ejemplo de modelo alternativo no hay

pero cuando se pide con tanta intensidad modelos alternativos oiga

señorías yo creo que la enmienda que hemos acordado con el gobierno no es para erradicar la enfermedad

también forman parte del sector forestal los propietarios

alguien que ha venido aquí a destruir nada son propietarios efectivamente se han transmitido

hectáreas de monte y ellos están gestionando el monte y es una actividad económica le guste o no le guste ya lo siento

eskerrik asko casi no iba a salir pero

mire que ha empezado bien la primera intervención ha sido muy interesante y me ha llamado la atención digo hombre parece que el profesor becerra empieza a aprender y ha hablado de prudencia ha hablado de

hay que trabajar con prudencia porque es un tema delicado donde hay muchos intereses y ahora me viene y me dice que la ue en una directiva prohíbe el cobre mire yo no la he visto jamás

estoy dispuesto a venir aquí públicamente y decir que existe pero desde luego el ministerio cuando está poniéndole pegas al gobierno a las diputaciones no es por la directiva es por otras razones no está hablando de la directiva el ministerio actual entonces bueno ya me gustaría verla porque he consultado con los máximos dirigentes del gobierno y puede que también ellos desconozcan esa directiva y entonces es una directiva un poco fantasmilla

permite hasta cuatro kilos por hectárea de cobre lo permite y la propuesta de las diputaciones es de ochocientos gramos por hectárea para que sepa simplemente

pero claro critica que queremos hacer un diagnóstico compartido los dos en sus enmiendas los dos hablaban del diagnóstico compartido

permítame señora lopez no voy a sonsacar nada que sea secreto

en que estábamos absolutamente de acuerdo yo le hice una pequeña corrección

otro modelo porque lo que no estoy dispuesto a que se hable de otro modelo porque sí es decir lo que yo quiero es que analicemos qué modelo queremos este otro o el de más allá

porque entendemos que es malo intrínsecamente no estoy dispuesto porque no es intrínsecamente malo

cada uno podemos tener nuestra opinión al respecto es verdad es subjetivo pero a mí me parece bien a usted no le parece bien al señor becerra le parece fatal

pero que estamos dispuestos a analizar ese modelo no a proponer directamente otro modelo pero bueno

de que en el último segundo les volvía a entrar el vértigo de compartir ideas de política en este caso forestal muy delicada en determinados ámbitos con el pnv pero bueno creo que con el tiempo seremos capaces de llegar porque creo

pero es una cuestión de trabajarlo con tiempo y a partir de ahí independientemente de la prudencia hay que trabajar en diagnosticar qué queremos pero tienen que saber una cosa la materia no es del gobierno es de las diputaciones es de las diputaciones

que es una labor que ejerce el gobierno la lth es contundente yo soy de lth hasta arriba

no voy a ceder es de las diputaciones otra cosa es que el gobierno puede ejercer muy bien con dificultades un trabajo de coordinación para que las tres diputaciones puedan ir juntas en esta materia pero es un trabajo de las diputaciones de hecho la solicitud para poder fumigar en determinadas zonas no la hace el gobierno la hacen las diputaciones al gobierno que el gobierno es puro tramitador de la solicitud

vayan a debatir esto en las juntas generales que es donde mejor pueden

me quedan algunas cosas más en el tintero me ha venido muy bien este debate porque esta fiebre se me ha quitado y estaría dispuesto a seguir otro par

pero simplemente recordarles que nosotros hemos pospuesto planificar estudiar tanto hacia dónde queremos ir como cómo podemos atacar la enfermedad y la enfermedad no solo se ataca con cobre o caldo bordelés

porque no se hace en estos momentos entresacas y eso hace que los pinos estén muy próximos los unos a los otros y la enfermedad se contagie mucho más rápido por ejemplo y a lo mejor hay que trabajar mejor en que el forestalismo sea más consciente de tener que hacer las labores y sin más

expresada por la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos

estas condenas involucran a una defensora de derechos humanos también diputada del congreso nacional condenada por el delito de calumnia constitutivo de difamación a dos años y ocho meses

e interdicción civil y un periodista sentenciado a diez años de reclusión no conmutable por seis delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias